y es que por mucho que se empeñe algún grupo de esta cámara en atribuirse algún mérito lo cierto es que este proyecto se inició con el lehendakari ibarretxe y tras una legislatura de gobierno socialista donde el proceso de acreditación estuvo prácticamente paralizado

intereses políticos o partidistas para centrarse en lo realmente importante

una legislatura entera perdida por el empecinamiento del gobierno socialista y del anterior director científico en construir un edificio mientras con absoluta desidia se descuidaba completamente el proceso de acreditación es decir lo realmente importante

de algunos representantes políticos de esta cámara que le acusaron de pretender paralizar el proyecto de dar un sopapo a la investigación científica y de pretender ser un freno a la llegada o a expulsar personas investigadoras entre otras acusaciones

mantuvo firme su compromiso por sacar adelante el proyecto de biocruces talde horien asmoa ez zen biogurutzetan egitasmoa aurrera ateratzea

se habían empezado a trabajar en la legislatura anterior zorionez

en primer lugar mi solidaridad y la del gobierno vasco por todas las personas afectadas por las inundaciones estos días bien

ha constituido uno de los objetivos principales del departamento de salud del gobierno vasco su reconocimiento supone un paso indispensable

que junto a biodonostia y otras infraestructuras de investigación

y por la innovación en el sistema sanitario en numerosas ocasiones hemos informado en esta cámara

para esta acreditación hoy me complace poder informar de este complejo proceso por ello

mi reconocimiento para los investigadores e investigadoras verdaderos artífices de la acreditación de estos meses de trabajo me gustaría resaltar dos aspectos que han resultado claves para el éxito del proyecto en primer lugar el cambio de dirección científica apostando por profesionales del hospital de reconocido prestigio y trayectoria y en segundo indispensable incorporación de la upv al proyecto y como consecuencia al patronato de biocruces hecho que se produjo en el año

pertsona horiei guztiei en la auditoría del instituto carlos tercero

según palabras textuales del propio ente acreditador al cumplirse el cien por ciento de los objetivos exigibles y el noventa y siete por ciento

porque como les he dicho estamos convencidos que los responsables del éxito son los profesionales que han trabajado en el proyecto

por las personas que llevaban tiempo en lograrlo desde finales del dos mil ocho como ha dicho el señor orbegozo biocruces

que nos ha tocado dirigir desde diciembre de dos mil doce a partir de ese momento un equipo conformado por personas del departamento de salud

ha trabajado coordinada y eficazmente hoy estamos ante el resultado de este trabajo un grupo de investigación sanitaria

puede ahora acceder a mayor financiación específica y tal como dijimos al inicio de la legislatura lo primero era disponer de un modelo organizativo de garantía para la investigación que no tenía y la acreditación para posteriormente plantear la ampliación de un edificio

y funcionalidad como han podido comprobar ustedes el edificio no era indispensable

zena sin duda la investigación en ciencias de saludad es uno de los retos de nuestro futuro

comunitario define la investigación industrial como la investigación planificada

y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos procesos o servicios que permitan mejorar considerablemente los ya existentes incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para la investigación industrial

considerando esto y atendiendo a todas estas referencias dentro de la documentación técnica y administrativa en la cual se evalúa los resultados conseguidos dice textualmente el principal hito del proyecto que es el

y el desarrollo de la nueva tecnología necesaria para su materialización se ha conseguido satisfactoriamente habiéndose realizado una primera presentación oficial de prototipo

doce en la sede de la comisión europea de bruselas por tanto

estaba completa voy más allá dice además para ello se han alcanzado los objetivos de diseño de las líneas de ensamblado

del proceso industrial seriado para la fabricación de cada uno de los módulos de componentes del vehículo y de los bancos de ensayo necesarios para el test y verificación de los componentes del vehículo

y además se han conseguido tres patentes como usted dice por tanto el vehículo se presento el veinticuatro de enero hay constancia además de que así se hizo en europa

quedan absolutamente cumplidos en cuanto a los objetivos de investigación se refiere

que ustedes siempre van un paso por detrás en el asunto de hiriko usted dice que

el único objetivo que hemos visto cumplido nosotros y nosotras es que el dinero público haya quedado en manos de los que han sido los promotores de manera irregular

o lo sitúa en los desarrollos técnicos le voy a hablar de algunos de ellos la robo rueda como usted sabrá todas las empresas automovilísticas la tienen desarrollada es decir todas tienen un modelo de robo rueda desarrollada usted sabe usted por qué nadie la utiliza porque la normativa europea no lo permite la normativa europea no

en esa patente en esa misma patente estamos pagando por algo que sabíamos perfectamente que no se iba a poder industrializar estamos pagando un conocimiento que las propias leyes

y fuera de europa no permiten y no lo permiten por la seguridad qué modelo de dar ayudas es este en el que estamos dando ayudas que incluso van en contra de los propios intereses industriales nuestros nunca se iba a poder hacer

la segunda de las patentes el plegado estamos hablando de un coche de dos coma cincuenta y tres metros la intención era dejarlo en dos y eso también era inviable y así lo dijeron los ingenieros que trabajaban en afypaida y eran inviable por varias razones entre ellas la económica

sobre todo porque daba muchos problemas en costes añadidos y en el peso y no se podía hacer en este modelo era imposible con lo cual todos esos desarrollos técnicos tecnológicos y demás de los que nos habla usted no eran ciertos no son ciertos nunca se iban a poder materializar usted nos está hablando de ideas pero que nosotros conozcamos las ideas había que plasmarlas el proyecto no era solo un proyecto de conocimiento y encima conocimiento que ya existe porque el plegado

qué estamos patentando aquí qué se está pagando y ya vamos a hablar de objetivos los únicos que intentaban o perseguían el cumplimiento de los objetivos

como en el desarrollo industrial eran los y las trabajadoras

pues quince de ellos están en los juzgados reclamándoles a aquellos que han cometido esta estafa esta trama les están reclamando sus salarios porque no les han pagado estamos hablando que con dieciocho millónes de euros todavía los trabajadores no han cobrado aquellos que sí perseguían cumplir los objetivos

usted nos puede decir más allá de repetirnos una y otra vez el tema de las patentes que se han conseguido los objetivos usted cree que el objetivo no era sacar el dinero

sacar el dinero llenar sus bolsillos y cerrar la empresa sin que quedase absolutamente nada y mientras los que sí perseguían cumplir los objetivos no pueden cobrar

me pongo muy pesada y lo repito porque parece que no se acaba de entender las ayudas del gobierno vasco dos mil diez

le he leído la convocatoria para qué era los hitos y los objetivos se cumplieron o no se cumplieron sí el coche fue posible se puso en marcha hay un prototipo se presentó en europa se plegaba tenía la robo rueda y tenía otros accesorios que también se cumplieron

eso no quiere decir y lo he dicho en más de una ocasión que se fallo en el momento de ponerlo en el mercado eso es cierto

me lo descubre usted ahora este coche evidentemente viene con una licencia

luego era una forma de ponerlo en marcha y no me confunda lo que es la empresa con el proyecto de investigación son dos cosas diferentes no

zera esan zenuenean no desoigo el pronunciamiento de este parlamento ahora bien tengo que entender y atender las razones también

se adoptan los acuerdos y usted ha mencionado el de la semana pasada sí pero usted sabe bien que la semana pasada se adopto una decisión sumando votos con unas razones y sus contrarias

es muy concreto y no hay lugar a dudas el parlamento vasco solicita al gobierno el cese inmediato de la directora general

mire señor lehendakari su gobierno no se está caracterizando precisamente por atender respetar y adoptar las medidas necesarias para cumplir con los acuerdos de esta cámara

no me lo permite nosotros pensamos que las resoluciones aprobadas derivadas de proposiciones no de ley han de ser respetadas y cumplidas por el gobierno la grandeza de la política y la democracia es precisamente poner de acuerdo a diferentes todos hemos oído alguna vez a los muchos ciudadanos decir aquello de pónganse ustedes de acuerdo y le voy a poner el acuerdo más importante logrado en la historia de nuestro país la aprobación del estatuto desde mi punto de vista fue alcanzado desde posiciones muy diferentes y podríamos decir que incluso contradictorias

para lograr a pesar de que se logro aquel gran acuerdo como fue el estatuto usted señor lehendakari en el pasado pleno se erigió en juez y evaluador

nos vino a decir que una vez alcanzado el acuerdo entenderá y atenderá en función de su análisis y digo yo de su interés por eso le preguntamos qué requisitos deben cumplir
los acuerdos parlamentarios para que contando con la mayoría de esta cámara sean respetados y cumplidos por su gobierno eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko

estatutario el acuerdo del estatuto de autonomía de gernika fue un acuerdo entre diferentes

un acuerdo entre diferentes que además en este caso es ley orgánica y aun a pesar de ser una ley orgánica se ha cumplido mire hace quince días afirmé y reitero

es y será una orientación importante para las decisiones del gobierno como lo son las consideraciones sobre cumplimiento de procedimientos y o de legalidad que toda decisión pueda suponer como también los condicionantes de estabilidad presupuestaria y usted lo sabe perfectamente señor unzalu

al gobierno le corresponde la responsabilidad de garantizar la estabilidad y continuidad en la gestión de e i te be y esta responsabilidad atiende un acuerdo del parlamento

y fíjese no es jurídicamente vinculante es una orientación condicionada a su viabilidad oportunidad y sostenibilidad

el lunes la directora general compareció ante este parlamento y ofreció sus explicaciones el martes el consejo de administración

y además no prosperó la solicitud de cese de la directora general que solo logró cinco votos en un consejo con veinte representantes

sobre el cese o no de la directora de e i te be no era mi intención mi intención era la de qué requisitos deben cumplir los acuerdos de esta cámara para que su gobierno los acate y los cumpla ese era el fondo de la cuestión usted ha transitado

del ejemplo concreto que le he puesto pero no era mi intención mi intención era decirle que desde nuestro punto de vista el día trece hizo una interpretación del valor que tienen los acuerdos de esta cámara resoluciones derivadas de proposiciones no de ley en las que lo fundamental

el ejemplo al que usted se ha sujetado esta hablando de una cuestión que no tienen nada que ver con los presupuestos no tiene nada que ver entonces lo que le digo

no creo que usted su gobierno tenga que evaluar la forma en la que se llega el acuerdo el texto al que se llega es lo importante el texto resultado de la negociación

texto no es lo importante insisto lo que nosotros consideramos es que

los acuerdos de esta cámara ya sabemos el carácter que tienen las proposiciones no de ley pero también queremos que la voluntad política de su gobierno se exprese cumpliendo

parece ser ustedes en función de la valoración política que hagan de los acuerdos de esta cámara los cumplirán o no los cumplirán y nosotros no estamos de acuerdo en eso no estamos

que lo fundamental lo que ustedes tienen que hacer el gobierno es cumplir con los acuerdos de esta cámara eskerrik asko unzalu jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor unzalu le reitero que

que no tienen carácter vinculante son orientaciones importantes para las decisiones del gobierno y le reitero también como he dicho en mi primera intervención como lo son las consideraciones sobre cumplimiento de procedimientos en este caso procedimientos

cuestiones de estabilidad presupuestaria que sabe también que comportan las decisiones parlamentarias que no tienen carácter vinculante es importante el por qué de las decisiones pero es importante también el para qué

y yo le reitero al gobierno le corresponde la responsabilidad de garantizar la estabilidad y continuidad en la gestión de e i te be y esto es lo que comprometo beraz

jaurlaritzaren babesa du horiek gauzatzeko las explicaciones ofrecidas por la directora general y los compromisos adquiridos ante la comisión de esta cámara

una nueva situación señor unzalu ha comprometido a analizar medidas para paliar la situación derivada de las treinta amortizaciones de puestos trabajadas o aprobadas

no ha sido revocado señor unzalu y la solicitud de cese no ha sido secundada insisto en que el consejo es el mejor aval para la gestión de la dirección de e i te be

lehendakari usted ha tomado la decisión de que el señor toña continúe como consejero de este gobierno

una sentencia le condena por incumplimiento de la ley llegados a este punto le queremos preguntar lehendakari

este consejero es modelo de integridad y ejemplaridad como cargo público eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea mire señora quiroga

la no comunicación de esta sentencia y me detengo aquí sentencia mercantil y le pediría que no confundiéramos con una condena penal

la sentencia habla de una inhabilitación parcial para un juzgado concreto

que no confundamos con una inhabilitación en todo caso la pregunta es

de promover la integridad y ejemplaridad de los cargos públicos pues le diré

y le digo que sí y lo que sea de ejemplar la actitud

desde que es consejero tendrá ocasión de demostrarlo todos los días eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

es que no pretendo dar ninguna lección porque entenderá que probablemente usted podría en ese segundo turno utilizarlo para

podría usted sacar aquí otros casos otras situaciones en las que no se hubiera dado un ejemplo de lo que creemos que tiene que ser la ética política pero mire es que

compartimos la necesidad de prestigiar la política la necesidad de que los ciudadanos vuelvan a creer en la política y que se prestigien las instituciones una institución también tan importante como la del gobierno

es que lo que ha ocurrido aquí es que usted ha llevado una situación

y usted ha metido con calzador a la comisión ética en esta historia

esa comisión ética es que no son competentes para tomar una decisión sobre este tema le afecta al señor toña que es un problema del señor toña es anterior

erkoreka ese es el primer punto que dice que no es competente pero sabe por qué porque dígame en toda la relación de ese código ético dónde aparece

público tenga que cumplir la ley dónde aparece no aparece porque va de suyo porque es un principio ético básico que un cargo público cumpla la ley y el problema del señor toña que es un problema que podía haber sido profesional suyo

el problema es que cuando usted decide que sea consejero tiene una proyección ya pública

que tiene que recurrir porque mientras tanto no estará cumpliendo con uno de los principios básicos de la política que es el cumplimiento de la ley por parte de un cargo público por eso lehendakari la decisión suya de mantenerle en el gobierno

tiene consecuencias para la imagen de una institución tan importante como el gobierno vasco y tiene también consecuencias para todos los vascos porque usted ha establecido dónde está el listón

por una cuestión de orgullo por una cuestión de soberbia suya de no querer reconocer que ha cometido un error

nos está arrastrando a todos a una situación en la que se ha cargado el código ético se ha cargado también la comisión ética porque dígame usted ahora

de su gobierno que se le aplica el código ético le dirán no a mí aplíqueme

porque con ese voy a salir muchísimo mejor y lo que es peor de todo esto lehendakari es que usted nos ha demostrado dónde está la medida de su ética política y en eso lehendakari nos arrastra a todos en esa decisión nosotros le pedimos que rectifique en esa

y se lo décimos y lo dejamos aquí bien claro porque creo que es nuestra obligación eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

le hacía a usted con muchísimo más rigor en las intervenciones y sobre todo en intervenciones de esta naturaleza mire

y tú más usted cree que todos somos iguales y sabe que no es mi estilo y vamos a hablar del señor toña en honor a esa integridad y ejemplaridad en la que creo le voy a pedir máximo rigor

el informe de la comisión de ética pública consta de diecisiete páginas

al caso plantea por unanimidad tres acuerdos que resumo y son los que yo le resumo no los que usted ha dicho señora quiroga

no estaba obligado a elevar su caso a la comisión de ética pública ya que son hechos que tuvieron lugar

léase las diecisiete páginas señora quiroga no haga usted referencia a que yo he llevado el tema a la comisión de ética cuando ha sido el propio consejero quien lo ha llevado

no contraviene el código ético y de conducta tercero

que recurra en casación la sentencia cinco barra dos mil quince

ha decidido presentar recurso el código ético y de conducta cumple con el objetivo de promover la integridad y ejemplaridad de los cargos públicos

los cargos públicos del gobierno vasco tienen suscrito su compromiso con el código ético la mejor prueba de ello es que el consejero decidió presentar el caso a la comisión aun cuando no estaba obligado a ello ya que los hechos tuvieron lugar antes de ese nombramiento señora quiroga si deja usted de hablar quizás me escuche

y acepte comprender también la verdadera razón de la cuestión

insisto la comisión de ética pública reprocha al señor ángel toña la no comunicación de esta sentencia mercantil

el consejero reconoció su error pidió disculpas le fueron aceptadas además decidió elevar esta cuestión a la comisión y ha aceptado la recomendación de presentar recurso como lehendakari he atendido todas las explicaciones tanto de la comisión de ética pública

señor lehendakari habiendo pasado dos años desde el inicio de la legislatura y comprobado el balance de su gobierno en lo que se refiere a la resolución de los problemas de la ciudadanía

creo que ha llegado el momento de que alguien le haga esta pregunta concreta y concisa y le ha tocado a upyd hacérsela

para seguir siendo lehendakari y lógicamente no me refiero a mantenerse en el cargo sin más sino de si se siente capaz de cumplir

y en concreto si se siente capacitado para resolver los problemas fundamentales de la ciudadanía gracias eskerrik asko

como toda parlamentaria y parlamentario me merece y atendiendo a la autentica realidad económica social judicial política e institucional

gracias señor lehendakari esperaba una respuesta incluso más corta sin embargo yo creo que
a la vista de los resultados y a la vista de su balance yo creo que usted no está capacitado para seguir siendo lehendakari habida cuenta los resultados obtenidos hasta ahora

las cifras del desempleo prácticamente se mantienen iguales a las existentes hace dos años la precariedad laboral se ha incrementado en estos dos años la precariedad laboral se ha incrementado también la desigualdad

la pobreza la pobreza en general la pobreza infantil y la pobreza energética además hay una serie de problemas adicionales que no se han resuelto como por ejemplo el asunto de lanbide que sigue siendo un absoluto desastre desde que el gobierno asumió su gestión problemas nuevos durante este tiempo problemas internos

consecuencia de los recortes sociales problemas internos

en e i te be donde sigue siendo directora general de e i te be una persona que ya no goza del apoyo de este parlamento este es el balance por lo tanto de sus dos años pero es que además se acumulan una serie de asuntos turbios que afectan directamente a su gobierno o al partido nacionalista vasco tenemos el caso

afines para financiarlos tenemos el caso de ibarzaharra donde personas del partido nacionalista vasco han sido imputadas tenemos el caso pinosolo

el juez ultima un auto para encausar a una treintena de personas por una trama corrupta en álava incluidas personas relevantes del partido nacionalista vasco tenemos el caso hiriko y tenemos el caso kutxabank es decir tenemos una serie de problemas

problemas nuevos es decir usted no ha resuelto ni uno solo de los problemas fundamentales de la sociedad la situación va y por cierto hemos conocido recientemente una encuesta donde se dice que solo uno de cada diez vascos cree que el gobierno vasco está solucionando las necesidades económicas y sociales

siendo veintisiete de setenta y cinco parlamentarios

tiene fuerzas para ello cree que va a resolver alguno de los problemas de la sociedad vasca sinceramente no le veo capaz de seguir siendo lehendakari el balance a fecha de hoy es absolutamente desolador si hasta ahora no ha resuelto los problemas de la sociedad los problemas fundamentales cómo vamos a pensar que a partir de ahora va a resolver

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro si lee las encuestas

y reproduzca aquí lo que dice también de usted la encuesta

en todo caso yo soy el lehendakari señor maneiro

los problemas de la ciudadanía vasca son mis problemas y voy a seguir dedicando todo mi esfuerzo y capacidad a tratar de resolverlos

y no voy a entrar en pugnas demagógicas y populistas señor maneiro yo no voy a participar en sus juicios sumarísimos apocalíptico catastrofistas de cuestiones además que no son competencia de este gobierno que es lo que usted

una y otra vez para intentar un desgaste del lehendakari de este gobierno

sus intervenciones estériles yo creo que no aportan nada a la sociedad como lehendakari voy a seguir liderando un gobierno serio un gobierno riguroso un gobierno cabal

y será señor maneiro la sociedad vasca ya que yo me siento capaz será la sociedad vasca la que en su momento llegado el momento

y mi confianza no en mí sino en la del gobierno en la capacidad del gobierno es plena y mi única obsesión es cumplir

con un programa de gobierno que estamos cumpliendo respondo pese a lo que usted dice con acuerdos plurales que han permitido sacar adelante los presupuestos

con el acuerdo marco de reactivación económica y de empleo respondo también con el acuerdo sobre la nueva formación profesional con la cartera de servicios sociales respondo también con el acuerdo en la flexibilización del objetivo del déficit respondo con el plan de inversiones respondo con el acuerdo en la concertación de tributos con el acuerdo en la reforma fiscal con el acuerdo en la lucha contra el fraude

acuerdos de país de los que usted está ausente usted está ausente

lo importante es la opinión de la sociedad vasca usted se enroca en sus posiciones

una interpretación de upyd como ultrapopulista

presidenta el lunes dieciséis de febrero supimos que la fiscalía de álava ha planteado una querella criminal contra los promotores del fracasado proyecto de coche eléctrico hiriko promotores que dispusieron de casi dieciocho millónes de euros en ayudas y subvenciones públicas casi quince millónes de euros procedentes del gobierno de españa cuando

del gobierno vasco los posibles delitos son ciertamente graves son los siguientes

fraude a la administración fraude de subvenciones blanqueo de capitales falsedad documental y apropiación indebida los querellados en

personas individuales son particulares pero alguno de ellos están claramente vinculados al partido nacionalista vasco

afypaida se constituye como vehículo que recibe fondos públicos y los distribuye entre las entidades mercantiles de la trama la juez ha admitido

a los seis empresarios demandados inicialmente el gobierno vasco dijo que no descartaba personarse en la causa contra los promotores algo que ya ha hecho la administración central después el señor erkoreka nos anunciaba que

aseguró que no hay motivo objetivo y justificado

en la causa judicial me parece interesante repasar sucintamente pero atentamente los antecedentes aurrekoak gogora ditzakegu

es upyd quien impulsa esta comisión de investigación y lo cierto es que ni el partido socialista ni el partido nacionalista vasco son favorables a ella algo quizás esconder y en todo caso lo que está claro es que nada querían aclarar la iniciativa tenía como objetivo acordar la constitución de una comisión especial de investigación sobre las ayudas las subvenciones y los créditos concedidos por las diferentes administraciones

e hiriko este era el trabajo que upyd quería que esta comisión

pudiera realizar sin embargo desde el inicio de los trabajos tanto el partido nacionalista vasco como el partido socialista de euskadi pusieron todos los impedimentos posibles para que esta comisión

eso se demuestra en sus prisas por cerrar los trabajos de la comisión

en las escasas horas que se habilitaron para presentar alegaciones o en el escaso día y medio que tuvimos para leer las alegaciones o enmiendas del resto de grupo una actitud por lo tanto poco colaboradora su reflejo en las vicisitudes internas del tribunal vasco de cuentas públicas finalmente se aprobó un dictamen que nosotros definimos en su momento como muy moderado

se quedó corto y fueron rechazadas todas las enmiendas de los grupos que querían ir algo más allá fueron rechazadas con los votos del partido nacionalista vasco y del partido

zuzenketa eta alegazio guztiei ere esto creo que también es importante recordarlo a partir de ahí

de conclusiones en relación a hiriko una de ellas se decía que el gobierno careció de una falta de visión estratégica

del proyecto hiriko todas las enmiendas de upyd en este asunto fueron rechazadas por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi algunas de ellas

como cuando planteábamos que el informe dijera que resulta totalmente sorprendente que unas asociaciones sin ánimo de lucro

o aquella en la que planteábamos que resulta sorprendente que una asociación sin ánimo de lucro afypaida pagara sueldos astronómicos a algunos de sus directivos resulta también sorprendente que el primer gestor de afypaida el señor iñigo antía con un sueldo de más de cien mil euros anuales no dispusiera de ninguna cualificación profesional ni experiencia en el campo o cuando propusimos que se incluyera en ese dictamen que resulta totalmente asombroso que en la práctica totalidad de las asociaciones y empresas implicadas en el proyecto guarden relación con el partido nacionalista vasco y que la mayoría de sus gestores

dirigentes o cargos públicos de ese partido también se votó en contra a través

de upyd en la que proponíamos que se incluyera en el dictamen lo siguiente no se ha demostrado que se planteara un desarrollo industrial de fabricación con un proyecto de viabilidad y financiación serios

una realidad en el futuro o cuando se planteó que los continuos cambios de empresas proveedoras e ingenierías en el consorcio hiriko

debieron alertar y provocar en el gobierno una mayor prudencia en fin fueron muchas las enmiendas planteadas por upyd que fueron rechazadas con los votos del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi muchas de estas enmiendas que fueran rechazadas ahora tienen todo el sentido del mundo

a terminar demostrando también proponíamos una enmienda para que ese dictamen dijera que el gobierno de españa presidido por josé luis rodríguez zapatero

dado que conllevaron la concesión de ayudas y subvenciones a hiriko sin existir por parte del ejecutivo central las necesarias medidas de valoración vigilancia y control que pudieran justificarlas a partir de ahí también se aprueban una serie de recomendaciones

sirve para instar al gobierno vasco a que formalizara la petición de devoluciones de las ayudas y subvenciones concedidas a afypaida resumo esto porque creo que esto evidencia que lo que pudimos observar en aquella comisión de investigación es que hubo un acuerdo claro

para que esa comisión no hiciera todo lo que tenía que hacer para conocer finalmente la verdad en todo caso en todo caso en fin queremos saber su opinión en relación a este asunto teniendo en cuenta

queremos saber si el gobierno vasco va a personarse en el caso

para recuperar las ayudas obtenidas de forma fraudulenta por las empresas promotoras del proyecto hiriko queremos saber qué medidas piensa tomar el gobierno para que hechos semejantes no vuelvan a repetirse queremos saber qué responsabilidad asume

hayan ido finalmente a manos privadas a personas relacionadas con el partido nacionalista vasco zure iritzia ezagutu nahi dugu

señor maneiro en lo que se refiere a la ayuda del gobierno vasco creo que lo he repetido en más de una ocasión pero se trata de una ayuda a un proyecto de investigación en concreto del programa etorgai se lo he comentado previamente al señor

se trata de un proyecto por tanto que tenía unos objetivos muy claros planteados en la convocatoria dos mil diez del programa etorgai

y son la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir

que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos procesos o servicios o permitan mejorar considerablemente los ya existentes es decir en ningún caso se dice que los productos procesos o servicios tengan que ser llevados a cabo dice que puedan ser útiles conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles

especialmente la validación de tecnología genérica eso es la convocatoria etorgai eso es por lo que la unión europea nos permite dar subvenciones donde existen fallos de mercado y riesgos industriales por eso se trata de programas en los que hay una importante cantidad de subvención eso es lo que dice la unión europea y por eso se le dieron las ayudas correspondientes

etorgai avalada por la unión europea repito como otros tantos programas subvencionales se dice que los conocimientos adquiridos las patentes y licencias en su caso son propiedad después del consorcio que los ha desarrollado y es así porque así lo avala la convocatoria en el caso concreto de hiriko evidentemente y lo vuelvo a repetir una serie de hitos y el principal era el del diseño fabricación de un prototipo de vehículo eléctrico que se llevó a cabo y ese vehículo eléctrico prototipo

el volante un tanto especial con el plegado fue presentado en bruselas con el señor barroso por cierto dentro de ese coche

de dos mil doce eso significa que los objetivos de este proyecto en cuanto a investigación repito que son las ayudas que corresponden al gobierno vasco

se trataba de un proyecto de riesgo es cierto por tanto en el año dos mil diez en lugar de dar automáticamente la subvención para los tres años de proyecto

evaluar la consecución de los objetivos para ese año se emitió el informe correspondiente y se dio la subvención para el año dos mil once lo mismo se repitió en el año dos mil once y se dio la subvención para el dos mil doce que es cuando apareció ya el prototipo del coche y donde dice además otro informe que para ellos han alcanzado los objetivos de diseño de las líneas de ensamblado tanto del vehículo como de las roboruedas del proceso industrial y demás que he repetido previamente

y hay que liquidar todas las ayudas y se observa que hay una pequeña parte que no se ha cumplido en ese proyecto con lo cual se solicita la devolución de esa pequeña parte de la ayuda de los dos millónes setecientos mil previstos previamente se solicita la devolución

por tanto se ha exigido y se ha seguido el proyecto de forma exhaustiva

como proyecto de investigación no tenemos ninguna causa objetiva

que a lo largo del proceso judicial si se demuestra que esas ayudas

y vayamos a solicitar esa devolución pero hoy no existen motivos objetivos

a personarnos en esa situación en ese proceso judicial porque insisto

está bien hecho otra cosa es que el proyecto de comercialización después haya sido fallido y entiendo que hay otra administración mucho más implicada que nosotros que tendrá que dar cuenta de lo suyo

y permítame decirle también señor maneiro que evidentemente todo lo que usted nos ha relatado otra vez de la comisión de investigación creo que quedó finalizada se votó aquí

ver la realidad que es la que le estoy relatando la realidad de un proyecto de investigación como tantos otros que hay en esta comunidad por cierto que la unión europea dice que somos la región de las que mejor lo hace porque precisamente cuanto mayor

mayor es la subvención que es lo que se tiene que hacer en la línea que lo estamos haciendo que hemos emprendido mejoras sí que todavía se pueden emprender más evidentemente y que hay que hacer un seguimiento exhaustivo de todas las ayudas y todo lo que se consigue con las mismas eso es cierto pero el objetivo

no es otro que el que cubrir un margen de riesgo importante un fallo de mercado es decir donde no hay nadie en el mercado sino esas ayudas serían incompatibles a nuestro juicio por tanto hoy no hay motivo alguno hoy para que nos personemos en esa querella no quiere decir que no vayamos a hacer el seguimiento de ese proceso de forma muy detallada y que si se produjera

lo haríamos como gobierno en ese caso pero hoy no resulta necesario eskerrik asko tapia andrea maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias consejera señora consejera se siente usted orgullosa de los resultados de este

que rodean a este asunto piensa usted que no ha habido errores

qué reflexión hace en relación a la querella presentada por el fiscal qué cree usted que puede haber detrás de ello qué opinión le merece

usted de verdad cree eso no le hace pensar que algo más hay detrás si echamos un vistazo

muchas de ellas personas vinculadas al partido nacionalista vasco muchas de ellas personas relacionadas con el partido nacionalista vasco qué reflexión tiene que realizar usted

que todas esas personas estén vinculadas al partido nacionalista vasco no cree usted que lo que aquí se ha producido realmente ha sido un trasvase de fondos públicos

a determinadas manos privadas por ser exactamente quienes eran yo creo que sí y creo además que es esto precisamente lo que en última instancia tendrá

porque fueron el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi en una primera instancia quienes se negaron a poner en marcha esta comisión de investigación porque tenían algo que ocultar y

en los trabajos realizados por esa comisión de investigación no facilitaron las cosas para poder saber qué había ocurrido sino todo lo contrario pusieron todos los impedimentos que pudieron para impedir el mejor trabajo posible esa es la realidad y claro no estamos hablando únicamente de los fondos públicos aportados por el gobierno vasco sino también de los fondos públicos aportados por el gobierno de españa y no podemos olvidar que ahí el partido nacionalista vasco tuvo un papel esencial cuando exigió

para este proyecto y ahí evidentemente el señor erkoreka por cierto tuvo un papel esencial por qué el partido nacionalista vasco considera este asunto como esencial para poder salvar al presidente del gobierno no tiene usted nada que decir al respecto más allá de decir que usted es simplemente consejera

por qué el partido nacionalista vasco puso tanto interés en que el gobierno de españa financiara este proyecto luego fracasado

del partido nacionalista vasco con las empresas las conexiones de este asunto con el caso de miguel las conexiones epsilon hiriko arakamendi como estrategia global del partido nacionalista vasco yo creo que todo esto se corresponde con una determinada forma de actuar que se ha producido

meses estamos conociendo más casos ibarzaharra pinosolo de miguel incluso kutxabank y algunos otros da la sensación que aquí lo que ha habido ha sido un trasvase de fondos públicos a determinadas personas que únicamente debían cumplir un requisito fundamental o al menos uno que es tener el carnet de un determinado partido político esa es la sensación que al final se tiene y yo creo que es lo que se tendrá que investigar yo creo que estamos ante un nuevo caso de corrupción soterrada y uso de dinero público en beneficio de determinadas personas del partido nacionalista vasco esto es lo que yo creo que

muchos casos creo que es un asunto turbio creo que estamos asistiendo al resumen de lo que ha sido la política vasca en muchos ámbitos durante las últimas

personas en contra de los intereses generales de la ciudadanía por eso yo creo que el gobierno tiene mucho que decir en relación a esta cuestión y desde luego creo que debería personarse en el caso y debería hacer todo lo posible para la recuperación de las ayudas pudieron utilizarse después de manera fraudulenta y creo que también esta cámara debería decir algo en relación a las actuaciones llevadas a cabo en su momento por el gobierno de españa

de la mayor transparencia posible y en favor de la regeneración democrática
que sigue estando pendiente en euskadi eskerrik asko

un proceso judicial dónde está la presunción de inocencia dónde quedan

otras tantas causas querellas y demás que se ha demostrado que no hay nada después vamos a dejar al juez hacer lo que hay que hacer aquí todavía no se ha demostrado nada

y no me haga hablar como jueza en lugar de como consejera

y doce por tanto de eso es de lo que yo tengo que responder no de otra cosa

en otros casos evidentemente de eso es de lo que estamos hablando no me pretenda marear la perdiz no me pretenda mezclar las cosas esto es

hoy no ha lugar y en cuanto al gobierno de españa evidentemente existían una serie de enmiendas puestas de forma conjunta con el partido socialista se presentaba una serie de proyectos y conjuntamente se analizaban y a partir de ahí la responsabilidad es de cada uno de los gobiernos entiendo yo porque son los que dan las ayudas y tienen que justificarlas y yo respondo de las del gobierno vasco insisto se ha demostrado que están bien

está usted intentando revolver confundir con una estrategia bueno

nos cuenta las mismas cosas de forma constante una y otra vez cuantas veces nos las va a volver a contar

una y otra vez contando las mismas historias intentando mezclarlo todo pero es que los presentes aquí ni somos tontos y creo que los que nos escuchan tampoco por tanto vamos a ser un poquito serios y vamos a ir a las cosas de las que estamos hablando esta cámara además ha trabajado en una ponencia ahora no me diga usted que tiene que haber otra comisión ha trabajado en una comisión de investigación cuantas veces quiere investigar lo mismo cuantas veces

ha habido una comisión de investigación se ha votado en este parlamento y se ha cerrado otra vez tenemos que abrirla por qué por qué si está en este momento dentro de un proceso judicial

y desde luego insisto hoy en día no hay nada que nos permita demostrar que nos tenemos que personar contra nada ni contra nadie porque los objetivos del proyecto de investigación son adecuados y ajustados a lo que se dijo que se iba a cumplir

porque sí esto está dentro de todo un proceso de cómo se hacen y cómo se justifican las ayudas y cuando usted quiera

a analizar todas las ayudas que existen todos los programas que existen y cómo se hace y cómo se van mejorando y adaptándose a lo que dice la comunidad europea y no pretenda mezclar cosas que no tienen unas con otras no pretenda mezclar esto es un proyecto de investigación y si usted quiere más detalles cuando quiera yo le cuento cómo funcionan las cosas pero por favor

y buenos días señor lehendakari el pasado mes de enero usted declaró en deusto forum

el empleo juvenil y la innovación este grupo parlamentario por supuesto como no puede ser de otra manera comparte el diagnóstico

con una comparecencia en la comisión pertinente por tanto esperamos que la estrategia económica que ha diseñado el gobierno vasco dentro de su programa euskadi dos mil veinte

y sobre todo de soluciones reales y contrastables a la situación laboral de la juventud vasca

son dos problemas del presente antes que retos como usted los definió

que demandan actuaciones en el presente observamos cierta dificultad en su gobierno por contextualizar los problemas es decir por introducir los problemas que afectan a la sociedad en su justa dimensión temporal un reto supone un objetivo o en su afección mas primigenia un empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafió para el que lo afronta pero esta definición tiene una dimensión futura

y nosotros creemos que debemos centrarnos en el año dos mil quince nuestro presente dos mil veinte queda demasiado lejos para los problemas reales de la juventud y de útil resolución exprimamos ahora el programa marco por el empleo y la reactivación económica de su gobierno comprometido con seis mil cuatrocientos setenta y cinco millónes de euros en tres años

su estrategia de crecimiento sostenible dos mil veinte demanda obviamente un espíritu de acuerdo y consenso

sin embargo cómo abordamos el problema del empleo juvenil desde una perspectiva de aquí y ahora en definitiva qué estrategia contempla el gobierno vasco para encarar en la actualidad
y de cara al futuro próximo los problemas de desempleo de los jóvenes vascos eskerrik asko rojo andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea señora rojo el hecho de que diga que es un reto no impide reconocer que en el presente sea un problema y además de un problema también un reto de presente la estrategia para generar oportunidades de empleo para la juventud es una

no es que sea un reto es un compromiso político y es un compromiso social presente y es un compromiso recogido en el programa de gobierno hemos tenido en consideración además los informes de la dirección de juventud y contado también con aportaciones

tiene su reflejo en acuerdos con el plan de formación profesional compartido con los centros o con el acuerdo con las diputaciones forales para fortalecer el entendimiento

en el marco del consorcio con las cámaras de comercio por lo tanto es una prioridad

en el debate de política general planteé el empleo juvenil como prioridad dos mil quince

creo que hay una coincidencia plena en la relevancia de este objetivo tanto para usted como para mí como lehendakari soy muy consciente de que tenemos mucho por hacer estamos avanzando en la atención especializada en la aplicación del programa europeo de garantía juvenil o en fortalecer el entendimiento ya sea en formación

en junior cooperativas estamos impulsando la primera experiencia laboral mediante el programa lehen aukera o la experiencia internacional en sectores emergentes

esta es la estrategia para favorecer el empleo juvenil en el que está implicado este gobierno en el presente eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí gracias otra vez presidenta señor lehendakari no niego que su gobierno está haciendo iniciativas es verdad usted las ha anunciado en cada lugar donde ha podido y además hace bien en ello lo que cuestiono son los resultados de las mismas que efectivamente cualquier gobierno responsable debe tener a la juventud no solo en un momento precario como es este

colectivos a los que atender pero creo que los resultados no están siendo adecuados

usted ha nombrado y que yo la verdad no pretendía nombrarles

de hecho en este parlamento presentó uno de los informes que han hecho en el tema laboral y verdaderamente son muy preocupantes los resultados que ellos plantean y el diagnóstico que hacen por otra parte tal como y como planteamos en la última comisión parlamentaria

con unas conclusiones verdaderamente preocupantes es escaso el porcentaje de jóvenes que encuentran empleo acorde a su formación el treinta y nueve por ciento de los menores de treinta años que tiene trabajo piensa que en el plazo de un año puede perderlo el cuarenta y cinco por ciento de los jóvenes no ve posible salir de casa de sus padres por lo tanto

proyecto de vida en cuanto a la emancipación y yo le quisiera preguntar qué frutos están dando las políticas de promoción

el ejecutivo vasco ha destinado durante dos mil catorce veintiocho millónes de euros a planes de apoyo a emprendedores juveniles formación promoción del talento

pero sin embargo cuál es el resultado real que poder ofrecer a la juventud vasca como solución por parte de un gobierno que dice que ellos son su prioridad es cierto que la lucha contra el desempleo juvenil

y también requieren de su tiempo de implantación pero no establezcamos retos incondicionales al paso del tiempo

lo condiciona la acción del gobierno no están obteniendo resultados señor urkullu y ahí es la respuesta q usted debe darles eskerrik asko rojo andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora rojo siendo que es una prioridad dos mil quince

y por lo tanto algo que ha comenzado el año dos mil catorce no creo que sea oportuno

la estrategia que yo he presentado tiene su reflejo en el presupuesto del año dos mil catorce y en el presupuesto también de este año también en el acuerdo marco de empleo y de reactivación económica mire

que nos marcamos hasta el año dos mil dieciséis el plan de empleo contempla medidas directas de apoyo al empleo juvenil por importe de ochenta y cinco millónes de euros que el impacto estimado es la creación directa de dos mil empleos para la juventud y la mejora de la empleabilidad

o de primera experiencia laboral y quinientos becas anuales de formación internacional son acuerdos firmados con ustedes señora rojo

los hemos evaluado juntos el gobierno está dispuesto a seguir sumando y ayer mismo volvía a plantear

creo que es momento no de hacer las valoraciones a corto plazo sino en esa senda de aquí hasta el año dos mil dieciséis o desde el año dos mil catorce hasta el año dos mil dieciséis aunando esfuerzos porque tras seis años de crisis

empezado a crear empleo que el primer paso se ha dado y que en ese sentido tenemos que profundizar beraz gazte enplegua lehentasun bat da guretzat enplegu planerako

señora urrea la pasada semana como he dicho antes en mi primera intervención participé no solamente en la comisión interdepartamental de esta semana sino que la semana pasada participé en el consejo de dirección de emakunde le puedo asegurar que la evaluación quinquenal

por eso cuando una empresa cierra reabrir el negocio resulta muy difícil

ante esta situación nos encontramos ante un gobierno que no tiene política industrial alguna y lo que es peor

está desaparecida sirva como ejemplo que el ocho de abril de dos mil catorce

pero esa cita a día de hoy no se ha producido la consejera se comunica con la sociedad mediante los diferentes actos empresariales a los que acude puntualmente

irakurketak egitea laburbilduta esta es la actitud que ha mantenido el gobierno vasco desde el principio de este proceso

cuando lo hacemos no ofrecer ninguna información y además rehuir un papel activo en la búsqueda de soluciones ese parece ser el rol del gobierno vasco

preguntándose qué más hace falta para que defienda los empleos de los trabajadores

toda nuestra política industrial va fundamentalmente dirigida a aumentar la competitividad en nuestro sector industrial

pero se trata en definitiva de un conjunto de herramientas disponibles para toda nuestra empresa y que gestionadas de una forma proactiva pueden hacer una empresa que sea mas o menos competitiva sin embargo hoy nos queremos centrar en las situaciones de empresas en momentos de crisis como usted bien decía y este tipo de crisis puede ser de dos tipos puede ser coyuntural precisamente derivada de una crisis mundial como la que hemos vivido

debido a otro tipo de situaciones problemáticas ya lo he comentado también en alguna ocasión anterior pero este tipo de situaciones son atendidas desde el gobierno vasco

que entiende en procesos de regulación o extinción de empleo valorando la normativa existente

y la proporcionalidad de las medidas que emprende la empresa y por otra parte

por tanto los dos departamentos actúan de forma conjunta en este tipo de casos los casos de empresas con dificultades de carácter coyuntural problemas sobrevenidos de carácter financiero comercial o productivo con una incidencia potencial grave son sistemáticamente analizados por el departamento a fin de determinar

o de intermediación frente a entidades financieras a clientes o a proveedores que permitan favorecer la solución coyuntural que se está produciendo en ese momento si por el contrario el caso de las empresas en crisis

estructural el departamento de desarrollo económico y competitividad requiere necesariamente la presentación de un plan sólido de reestructuración

importante una apuesta económica importante por parte de los empresarios y con un acuerdo de la parte social estas medidas se recogen en un programa específico

viabilidad implicación de la empresa y acuerdo de los trabajadores y en ese caso entra la ayuda del gobierno pero se encuentra limitada a empresas pequeñas y medianas

se enfrentan a situaciones de insolvencia y concurso de acreedores las actividades del departamento se centran en favorecer los acuerdos necesarios que posibiliten el levantamiento de ese concurso

la manera de mantener la actividad buscando un inversor alternativo que tenga

en todo o en parte tenemos por otra parte además el caso de grandes empresas y multinacionales se trata de un caso especial

porque en euskadi contamos con empresas con presencia de este tipo algunas de ellas con gran arraigo y gran implicación en el país y que realizan su función como si se tratara de una empresa local y por tanto a ellas

de la misma manera que con el resto puesto que están trabajando con una responsabilidad social y una implicación territorial importante pero hay algún caso concreto y usted hace referencia a alguno de ellos

sin razones objetivas suficientemente demostradas en estos casos como principio general el departamento trabaja bajo la presunción de que se trata de grandes multinacionales que pueden aportar soluciones alternativas al cierre porque son decisiones que se toman lejos

en la mayoría de las ocasiones sin tener en cuenta la competitividad de la instalación concreta ubicada en euskadi simplemente con el objetivo de atajar pérdidas que se están produciendo y que desde luego es posible encontrar soluciones alternativas

y no cejamos hasta que ellos presentan una solución alternativa porque consideramos que pueden y deben ofrecerla en estos casos tratamos además de escuchar

que son los que mayor conocimiento tienen de la empresa tratando de buscar esa alternativa concreta

si no fuera posible encontrar esa medida de reversión de la decisión de marcharse pues porque no se pueden encontrar medidas de ajuste que incorporen

la segunda opción que se plantea es la de la venta de la actividad y sucesión a inversores que tengan proyectos sólidos para ubicarse en esa empresa y darle continuidad

al menos la puesta en marcha por parte de la empresa de un plan de empleo concreto y de un compromiso que incorporé medidas de incentivación a la contratación y de formación que minimice el impacto de la decisión de cierre esto es lo que usted denomina

el conjunto de estas actividades suponen un volumen importantísimo un volumen enorme de trabajo de centenares de reuniones y contactos a todos los niveles con los comités de empresa con empresarios con inversores posibles con proveedores con entidades financieras esto es lo que usted decía lubakian sartu balu ba lubakian sartuta dago talde oso bat tenemos específico que evalúa cada uno de los casos que propone las medidas adecuadas y que trata de buscar la solución a cada una de las situaciones y es una labor necesaria e importante a la que dedicamos muchísimos esfuerzos que no siempre consigue resultados pero que algunos de los casos que se han tratado en esta cámara como las de fundiciones san eloy

el de fagor o el de kider han sido posibles tratar de no cerrar esas empresas y que continúen en su actividad son muchas más pero desde luego

se trata de una solución que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y como usted ha podido observar desde luego metodológicamente bien estructurada no se trata de actuaciones sueltas de actuaciones individuales sino de una metodología muy clara de funcionamiento y solamente por responderle a dos aspectos concretos evidentemente

y habla de que ciertos sindicatos dicen que asisto a muchos actos es cierto pero también tengo muchísimas reuniones privadas

creo que es más importante trabajarlo de forma concreta y en cuanto al caso concreto de condesa evidentemente también hemos trabajado con los trabajadores y por cierto

se haga con la empresa era su opción prioritaria a pesar de que le voy a decir que no era nuestra primera opción como gobierno sin embargo apostamos por la que ellos consideraron más importante

en facilitar que esa apuesta que ellos hicieron en su momento se conduzca se reconduzca si hay problemas y se llegue a una solución pero quiero insistir en que era su opción
prioritaria y nosotros trabajamos porque saliera aun no siendo la prioritaria del gobierno eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

que usted hablaba de un procedimiento denominado reindustrialización que según usted

habitual en europa pero que se pone en práctica por primera vez en euskal herria con la empresa candy señor casanova de verdad la historia no ha comenzado hoy ni ayer el procedimiento de reindustrialización vinculado a zonas especialmente afectadas por la crisis a empresas y demás

en este país desde los años ochenta en los ochenta en los noventa y ahora el procedimiento de reindustrialización al que usted hacía referencia

si no hay procedimiento para poner en marcha la empresa lo que se exige

es un plan de empleo y de formación que permita reactivar de otra manera esa empresa eso es lo que usted denomina plan de reindustrialización y desde luego se ha llevado a cabo en muchas empresas son múltiples los casos y los ejemplos que le puedo poner y le voy a poner el último y el último es el de la propia fagor electrodomésticos se incorporan los dos aspectos

eso es un plan de reindustrialización por tanto no ha aparecido hoy existe desde hace mucho tiempo en el caso de candy concretamente este departamento requirió a la multinacional

ellos dijeron que se marchaban a la tercera que ni iban a seguir con la actividad con menores costes ni iban a buscar un nuevo inversor sino que se marchaban por lo tanto les requerimos

y que pusiera a disposición de ese proyecto los activos industriales y los recursos necesarios además les pusimos en contacto hicimos el trabajo con una empresa especializada en este tipo de actuaciones que ya ha trabajado en otras actuaciones en gipuzkoa no voy a dar el nombre éxito en otras en euskadi y desde luego a nivel estatal que es una empresa especializada únicamente en hacer ese tipo de actuaciones y fuimos exigentes con la empresa

perfecto nosotros no vamos a ser el obstáculo que va a impedir que esa solución sea real sabe la diputación de gipuzkoa porque lo

que estamos dispuestos a una total colaboración como lo hemos estado en otro ejemplo en gipuzkoa también en ts fundiciones donde el trabajo conjunto ha sido mucho más sencillo de hacer

los trabajadores la empresa y en este caso la diputación de gipuzkoa como institución saben que nos tienen a su total disposición para colaboración

otro tipo de actuaciones diferenciadas en este proyecto que no se han producido en otros que no voy a entrar a valorar porque lo que nos interesa a todos es que eso sea una realidad

y sabiendo que esa empresa que pusimos a disposición puede hacer ese trabajo y puede hacer que aparezca un proyecto porque el tiempo es limitado y lo que nos preocupa de verdad es que

queremos ser colaboradores y proactivos lo saben todos y estamos a total disposición yo no voy a hablar en los medios prefiero trabajar para que sea posible la solución

besterik ez dugu esaten tal como comentaba este gobierno argumenta y defiende y ha argumentado y ha defendido en diferentes ocasiones que es necesario explorar para conocer la potencialidad de los recursos existentes porque en este país en este pequeño país los recursos energéticos autóctonos precisamente no son los disponibles no son los mayores y lo que queremos es que se haga con las máximas garantías ambientales

pero explorar para conocer y conocer para decidir sería a nuestro juicio una irresponsabilidad tomar decisiones previas y precipitadas en uno u otro sentido sin disponer de la información técnica necesaria y por eso creemos que es necesario saber lo que hay

a la agilización de plazos y demás evidentemente estamos a favor de que exista una agilización de plazos para que se pueda llevar acabo toda la exploración necesaria pero desde diciembre de dos mil trece posterior a la aprobación de la estrategia la ley ambiental

a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y no nos lo queremos saltar estamos a favor

pero en cualquier caso este gobierno está y suscribe plenamente que se aplique la política más garantista posible a nivel mundial a este respecto

pero con las máximas garantías con la máxima que pueda existir a nivel mundial y por supuesto quiero destacar que es evidente

la verdad a la ciudadanía ustedes exploran quieren explorar para explotar y la decisión está tomada y lo creemos que es así y le voy a decir por qué

en primer lugar porque la estrategia energética dice claramente la simplificación

y lo dice la estrategia energética y está escrito porque eso viene a colación de unas reuniones que el señor vicuña

en aquella época tuvo con una empresa heyco americana que se dedica a fracking y allí viene recogido

por lo tanto creemos que esas decisiones ya están tomadas y son para la explotación también lo creemos porque hay doce millónes este año

dos años para explorar y también creemos que para explotar treinta millónes de euros para poner en marcha la maquinaria del fracking en la comunidad autónoma vasca

para que analice los incentivos para la exploración y explotación de hidrocarburos y eso digo ustedes porque lo ha hecho

y también lo pensamos porque ustedes juega con las palabras pero cuando se reúne con los empresarios lo dicen claramente el gobierno vasco

una oportunidad de negocio y usted dice en esa reunión el sector oil gas va a ser uno de los ejes donde se van a abrir nuevos mercados solo en la exploración y dice el señor viceconsejero el gas no convencional podría dar una ventaja competitiva que ahora mismo no aprovechamos

competitividad hablan ustedes de competitividad hablan ustedes de mercado

y en ningún momento no hablan ustedes del impacto ambiental y de la nula reversión de costes que esta

por lo tanto nosotros creemos que la decisión está tomada y que ustedes la han tomado a favor de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional de todas maneras una última pregunta cuando exploren

qué resultados van a obtener qué es lo que van a tener en cuenta a la hora de decidir para explotar o no explotar

señores consejeros hiriko hiriko de nuevo las respuestas al señor lópez

más dimensiones todavía que se pueden preguntar al gobierno sobre la cuestión

y sí que nos damos cuenta de que hiriko no es lo que parece es lo que es y a veces nos recuerda un poco todo esto

la verdad está ahí fuera y a veces se decía también como otra de las frases de esa serie

apoyadas por exclusivamente dinero público que han tenido una función empresarial un fracaso empresarial absolutamente con dinero público ya hemos visto cuál ha sido la actitud de la fiscalía de álava en relación con el fallido

muy grave ha pasado con dinero público y esto es un duro golpe para nuestra política industrial para nuestras empresas para nuestra imagen

empresarial vasca se pueden resentir gravemente con este tipo de cuestiones y en ese sentido nosotros queremos preguntarle qué va a hacer el gobierno vasco para limpiar la imagen empresarial vasca tras la dimensión judicial de los escándalos epsilon e hiriko

gobierno vasco responsabilidad in vigilando y de la correcta marcha de nuestras empresas señora consejera muchas gracias

eskerrik asko presidente anderea señor barrio empezando por el final

me gustaría ser responsable de todas pero me parece que es imposible ni la presidenta del consejo de administración ni cosa parecida les ayudaré como siempre se ha hecho en este gobierno con todos los instrumentos y toda la ayuda que pueda ser posible para que sean viables competitivas que puedan hacer nuevas inversiones nuevas instalaciones y en momentos de dificultades como he respondido previamente estemos a su lado a parte de ahí creo que

en segundo lugar como le he contestado al señor casanova en lo que respecta al gobierno vasco no tengo ninguna duda de que las ayudas

porque los resultados están ahí y no me voy a volver a repetir porque resulta un poco cansado volver a repetir lo mismo

está en este momento en vía judicial y de nuevo le repito señor barrio dónde queda la presunción de inocencia acaso vamos a adelantarnos a lo que va a ocurrir en ese proceso judicial cuántas querellas y cuántos procesos se han puesto en marcha se han puesto en manos del juez

vamos a dejar que se trabaje y en caso de que sea necesario este gobierno se personará hoy no es la situación y quien pretende confundir y mezclarlo todo señor barrio es usted

quién está igualando un posible problema un presunto problema con el conjunto

realmente competitiva reconocida en el mundo por su buen hacer quién lo está enturbiando usted con esta pregunta usted con esta pregunta no hay en ningún caso ningún duro golpe ni cosa por el estilo primero porque ni se ha demostrado primero porque vamos a dejar trabajarlo en vías judiciales

señor barrio este gobierno va a seguir haciendo lo que ha hecho durante tanto tiempo durante treinta y cinco años estar al lado de la empresa poner en marcha todas las ayudas que sean necesarias

instrumentos de financiación que promuevan nuevas inversiones y nueva generación de empleo eso es lo que vamos a hacer y no pretenda que vaya a cambiar mi política creo que esa es la adecuada
se ha demostrado que es así y ahí vamos a continuar eskerrik asko tapia anderea barrio jauna zurea da hitza

gracias presidenta yo claro que quiero que cambie su política para

los de epsilon e hiriko claro que lo pretendo yo ya le he comentado antes

resultado ha sido un fracaso empresarial un fracaso empresarial sin precedentes una primera andadura una primera andadura mínima de investigación además de investigación no propia sino apoyada en la compra de la investigación y del proyecto y después un fracaso en homologación

y eso eso ustedes lo tienen que reconocer y se tienen que implicar en esta cuestión en estos dos fiascos empresariales que han sido últimamente no hay más que leer la prensa y los comentarios de la prensa la sepia y la blanca es decir

y ustedes desde luego se tienen que implicar el tribunal de cuentas de españa ahora a raíz de la

se va a implicar y ya ha dicho que en su programa dos mil quince la fiscalización de todas las ayudas subvenciones económicas o sea ahí será un buen dato desde luego que hace falta como otras cuestiones pero ustedes ustedes señora tapia se tienen que implicar se tienen que implicar como se implicaron ustedes además ustedes dos

implicaron en su día en dos mil nueve en dos mil diez en dos mil once con las enmiendas que presentaron a los presupuestos como el pnv se implicó en su día y ahora

fueron parte del problema todas estas cuestiones por lo que hemos visto dos enmiendas nueve millónes de euros

vamos a ver estos se implicaron en su día y ahora les pedimos que se impliquen porque el correcto desarrollo de esta cuestión y de recuperar todo esto es lo que va a dar

para la empresa vasca de verdad ustedes yo creo que están escurriendo el bulto y no lo deben hacer muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

no del proyecto de investigación que financió el gobierno vasco son dos cosas realmente diferentes aunque usted pretenda mezclarlas en segundo lugar usted dice que ahora

el gobierno del estado se ha dado cuenta ahora y ha puesto en manos del abogado del estado

ahora dónde estaba la fiscalización y el seguimiento de esas ayudas desde el año dos mil diez dónde han estado el gobierno vasco analizó

y si se cumplían los hitos dónde ha estado el gobierno del estado si hasta ahora no se ha dado cuenta igual cada uno tendría que mirarse hacia su casa y analizar exactamente

la diferencia es clara en este caso el gobierno vasco hizo el seguimiento exhaustivo de ese proyecto de investigación y ahí no hay irregularidad no demostrada hasta el momento insisto y a partir de ahora veremos no busque la foto señor barrio no busque la foto en este momento cuando hace unos años

toda una serie de personas de su partido no ponían en duda el proyecto en ese momento se sacaba la foto como el más entusiasta al lado del vehículo eléctrico de hiriko

el diputado general de álava están en unas fotos no me verá usted a mí en una de esas fotos ustedes en aquel momento eran entusiastas de este proyecto dónde ha estado su seguimiento dónde ha estado aplíquense el cuento y sigan el proyecto desde el principio este gobierno lo hace siempre y con todos los proyectos

consejera hace diez días la escuché anunciar durante su intervención un foro económico en bilbao

un plan de ayudas a la inversión industrial productiva en dos zonas declaradas desfavorecidas por la unión europea la margen

en gipuzkoa sin embargo usted rehusó dar más detalles sobre el contenido del plan escudándose

de la comisión europea y señaló que podría estar aprobado en verano por eso le pregunto para completar esa información qué objetivos persigue el gobierno con ese plan de ayudas a la inversión que usted ha afirmado que está preparando para las comarcas de la margen izquierda

señor reyes como usted bien decía la política comunitaria de desarrollo regional se plasma en diferentes reglamentos

y sobre todo se basa en discriminar aquellas zonas que son más desfavorecidas

tratando de promover esa industrialización y esa generación de empleo que lo que conlleve es un equilibrio territorial

periódicamente un mapa de ayudas regionales a fin de promover ese desarrollo equilibrado en cada una de los territorios en cada una de las regiones

donde los niveles de ayudas si existe un problema se pueden dar de forma más intensa salvo en determinados municipios como eran

no se podían ayudar a la implementación de proyectos de inversión de grandes empresas sino solamente de pymes e insisto en unas zonas muy concretas

es decir en dos mil catorce la comisión europea comunicó un nuevo mapa de ayudas regionales

y que amplía el número de municipios del país vasco que permite aplicar esos incentivos de inversión y además amplía el objeto es decir no solamente pymes sino lo que se denominan

los municipios autorizados ahora son los siguientes son sestao ortuella trapaga abanto muskiz

barakaldo alonsotegi y erandio y en gipuzkoa renteria pasaia

el desarrollo armónico y equilibrado de las diferentes comarcas de euskadi desde luego es un objetivo que

y pretendemos llevar a cabo y poner en marcha este tipo de ayudas específicas para lo que estamos trabajando estamos

a la unión europea para que sea autorizado pero sí le puedo adelantar algunos aspectos concretos que estamos trabajando para empresas

las ayudas equivaldrán hasta el diez por ciento de la inversión nueva que se haga y para las pymes puede llegar hasta el veinte por ciento eso es vamos a decir a grandes rasgos lo que cubre la ayuda regional que en este momento

puesto que el mapa que ha realizado la unión europea lo basa en datos de desempleo de dos mil doce y en consecuencia no aparece ninguno de estos municipios

municipios empresas pequeñas y también de mediana capitalización

en esos lugares que podemos considerar más desfavorecidos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea reyes jauna zurea da hitza

ya consejera pero eso no es explicar el proyecto que es lo que esperábamos hoy aquí

de bruselas porque el dinero lo pone el gobierno vasco y la única información que me ha dado es que las ayudas se equivaldrán en las grandes empresas al diez por ciento sí y en las medianas se puede incrementar hasta el veinte por ciento las pequeñas hasta el treinta por ciento y la inversión máxima admisible son cincuenta millónes las directrices las conocemos

diga un aspecto de las directrices que todos ya conocemos usted conoce por lo tanto cuáles son los márgenes con lo que cuenta a la hora de articular ese plan de inversiones entonces por qué no nos dice lo importante cuando hace una promesa del tipo que ha hecho para comarcas

cuánto dinero está dispuesto a poner el gobierno vasco sobre la mesa para esas inversiones

es la intención política y dentro de los márgenes que conoce perfectamente de qué partida presupuestaria sacará ese dinero

qué criterios fijara usted para orientar la naturaleza de las inversiones que también es importante o si la creación de puestos de trabajo o la innovación aparejada

van a modular de alguna manera la cuantía de esas ayudas es decir cuestiones básicas que hay que establecer si alguien esta finalizando como usted dice

en esas zonas desfavorecidas por qué no nos lo cuenta por qué no concreta cuando pueda y deba adelantar al menos de forma sumaria el contenido y los objetivos del plan

a nosotros todo eso que debe decir y tiene que saber y no dice huele a una promesa electoral que puede quedarse en poco

que usted diga de verdad ahora cuánto dinero va a poner en juego en qué condiciones de dónde lo va a sacar a dónde lo va a dirigir eso que tiene que saber si esta acabando el proyecto que quiere poner en marcha y una curiosidad si me permite consejera cuándo se ha dado cuenta de que esas comarcas tienen esas necesidades cuando ya hace un año

la excepción para que esas ayudas sean posibles para terminar no es la primera vez que se lo digo en esta tribuna pero creo que tiene que dejar de lado

esas giras publicitarias y gestionar más y en estas comarcas concretamente es verdad que se ha empezado a hacer algo en el marco de los planes de empleo

que hemos dado los socialistas al trabajo a la inversión en el empleo en esas comarcas pero estas ayudas que son unas inversiones

debemos de saber si es verdad o no lo que está diciendo y en qué términos

señor reyes siempre que hablamos de implantaciones nuevas industriales en este caso como usted bien dice se ha leído el mapa de ayuda a regionales y no podía esperar otra cosa de usted porque se suele leer con detalle las cosas

productivas es decir qué vamos a primar pues como siempre

de empleo de una cierta calidad evidentemente ligado a una inversión con una participación de una innovación tecnológica importante

presentamos es verdad que no hay una partida concreta porque todavía no sabíamos si íbamos a ser capaces pero sí está en el texto

barajando a través de los presupuestos de los que dispone el departamento para hacer inversiones en empresas el poder activar al rededor de ocho millónes de euros para este año para nuevas implantaciones

gainean lau koma zazpi para nosotros esta encuesta tiene un gran valor que nos dice cómo perciben los destinatarios el servicio que se les presta

y no quiero hacer más valor de ello siempre muy altas es verdad

tales niveles de satisfacción en un servicio público no se aprecia por tanto un deterioro en la prestación de la teleasistencia por lo menos tal y como lo dicen los usuarios

que es la sociedad pública del gobierno vasco que depende del departamento de salud que tiene encomendado el servicio y que contrata la prestación por ejemplo

entrantes desde el inicio del servicio todos los meses se alcanza el cien por ciento segundo que el ochenta por ciento de las llamadas sean atendidas en menos de veinte segundos ba bai belen andrea

se ha llevado a cabo una renovación del parque de tecnología heredado estaba fuera de garantía y eran modelos obsoletos se han sustituido los equipos cuya fecha de fabricación era de dos mil cinco

y las anteriores en la actualidad se cuenta con treinta y dos mil doscientos diez aparatos que corresponden a los dos modelos más avanzados del mercado

se prestan servicios de teleasistencia avanzada se instalan detectores de humo y de gas estos sistemas

ahora se utilizan en todo nuestro ámbito competencial a día de hoy llega alrededor del quince

aunque en este territorio se está incrementando notablemente su instalación para conseguir su homogeneización al respecto

antes de la asunción de la competencia por parte del gobierno vasco la coordinación con el sistema sanitario ha permitido por ejemplo primero que se hayan realizado

con un aumento del veintisiete por ciento respecto del ejercicio anterior

en segundo lugar se han dado setecientos setenta y cinco citas de atención primaria cursadas a través del servicio y con ello se ha producido un aumento del trece por ciento

un grupo de personas usuarias ha recibido un detector de caídas importante para las personas mayores integrado en el pulsador que permitirá realizar un análisis de dichas acciones se han realizado setenta mil llamadas de seguimiento informativas de la campaña de vacunación contra la gripe se podrían aportar más ejemplos

a avanzado y mejorado mucho en estos años por otro lado con relación a las condiciones laborales

una cifra absoluta que se ha venido manteniendo estable y es importante destacar que con el paso del tiempo se ha verificado un aumento del personal fijo en plantilla con la complementaria disminución del personal eventual

el personal subrogado de la empresa igon que era la prestadora del servicio

es decir condiciones económicas y sociales como permisos y descansos además de todo aquello que es mejorable en el actual convenio de aplicación

la empresa facilita el horario de nueve cero a catorce cero y de catorce cero a diecinueve cero para aquellas personas que necesiten dicho horario para conciliación familiar

a todo el personal de apoyo al servicio el número de horas de formación que se impartieron al personal de la plantilla el año pasado fueron

dos mil trece en lo concerniente a horas extras cualquier exceso horario debido a atenciones de emergencia

en tiempo a los trabajadores se han tomado otras medidas no previstas en el convenio actual como mejorar las condiciones del personal

esto se ha hecho desde septiembre de dos mil doce hasta septiembre de dos mil catorce

once por ciento del salario base se han introducido de manera creciente nuevas tecnologías para el apoyo y el desarrollo del trabajo

del personal teleoperador y del personal técnico de las unidades móviles por último se ha realizado una adaptación de los puestos de trabajo para asegurar que las personas con discapacidad puedan desempeñar las funciones encomendadas

y todos los procesos negociadores son difíciles entre el personal y la empresa y que hay desencuentros y discrepancias entre unos y otros nosotros como no puede ser de otra manera además siendo responsables del servicio y autoridad laboral en este caso también estamos tratando

ese conflicto de manera que satisfaga los intereses de los trabajadores en el contexto de nuestras competencias y posibilidades